no era mi intención de entrar a la anécdota pero señora celaá el partido nacionalista vasco no ha hecho ninguna cura de realismo porque a pesar de no haber estado tres años y medio en el gobierno

siempre ha sido consciente de la realidad que vive el pueblo vasco eskerrik asko eskerrik asko mendizabal andrea zuzenketarik aurkeztu

ordezkariak dauka hitza sí gracias

decir que votaremos en contra de la propuesta original y que votaremos a favor de la enmienda transaccional firmada por grupo socialista grupo popular

perfectamente razonable este tema ya está discutido en varias ocasiones en este parlamento todo lo que se recoge en esa transaccional y todo lo que han dicho los grupos que lo han firmado

para decirle a la señora ubera que nos parece que no es bueno que no es razonable abordar un asunto como el de la situación de los comedores escolares sin datos reales sin aportar

real de la situación hacerlo con demagogia o con propuestas irreales imposibles de llevar a la práctica en este momento creo que no es

productores vascos tampoco creo que sea la manera de abordar este asunto yo desde luego creo que los problemas

a las políticas de label etcétera yo creo que hay otros departamentos que tienen que abordarlo con medidas concretas creo que no es el sistema educativo ni la situación de los comedores escolares

usted que responsabilizar ahora de resolver problemas

creo que usted sabe perfectamente que es un brindis al sol su propuesta es en este momento irrealizable y además no es compartida por la mayoría

para decir también que peor me lo pone señora mendizabal porque si su

está al día y con realismo acerca de todos los pormenores que ocurren en este país entonces qué hacía defendiendo otro modelo en el año dos mil diez y en el año dos mil once

esto me parece todavía peor por tanto sigo insistiendo

ustedes están teniendo una cura de realismo a la llegada al gobierno no sabían ni lo que había ni lo que hay

y la están teniendo y desde luego señora ubera también he de decirle a usted que realmente está usted presumiendo que cuando las cuestiones se abordan a gran escala no hay cuidado ni de la formación ni de la educación y yo le digo que una cuestión es preservar los productos vascos que es algo

se contiene y otra cuestión muy distinta es que los monitores

nosotros creamos como unos quinientos y pico puestos de trabajo de manera indirecta obviamente con las empresas de catering simplemente en nuestra época

esas personas tienen formación y esas personas están formando a alumnos

qué garantías jurídicas de contratación

podemos tener en aquellos centros que con una magnifica voluntad los padres y madres de familia asumen el servicio complementario a la educación porque no es un servicio de educación es un servicio complementario a la educación de comedor para

por ejemplo por tanto lo que nosotros precisamos y garantizamos aquí es la garantía jurídica de que las personas y los bienes están bien contratados de acuerdo a los requisitos de contratación legal la garantía sanitaria y la garantía educativa y desde luego queremos salvaguardar la calidad

zerbitzuan mugatzen la única cura de realismo que ha hecho el partido nacionalista vasco es tener la sorpresa al saber que su gobierno no ha hecho lo que decía o prometía

una prioridad y lo debe ser para cualquier institución para cualquier gobierno especialmente para cualquier representante público hoy

es también una manera de medir la calidad de vida de los ciudadanos y por tanto debemos estar especialmente vigilantes y especialmente atentos

en que ese objetivo de la seguridad sea también asumido como un objetivo compartido por todos también en esta cámara la seguridad debe basarse en diferentes ámbitos para ser medida algunos de ellos son fácilmente medibles hay datos hay datos objetivos que periódicamente son provistos por diferentes analistas por diferentes instituciones en relación a qué es lo que pasa a cómo evolucionan diferentes ratios a cómo mejora o empeora la calidad de nuestra seguridad en nuestras calles en nuestros barrios en los diferentes municipios también

pero también hay que tener en cuenta otra cuestión la seguridad y en esto quienes

quienes conocemos la realidad de las cosas de todos nosotros que

cuál es la percepción que los ciudadanos tienen de la seguridad hay que entender que también en materia de seguridad hay sensaciones y hay percepciones

hacia una seguridad mayor o peor también hace que la sociedad mejore o empeore su nivel de preocupación en relación a este ámbito

ambas cuestiones los datos son importantes las percepciones lo que se percibe por parte del ciudadano a través de los medios de comunicación a través de la sociedad a través de lo que uno visualiza o siente directamente en las calles de nuestros municipios y ciudades absolutamente importante quiero empezar dejando claro que esta iniciativa no pretende generar alarmismo alguno es más yo diría que

inseguros no tenemos un problema acuciante en esta materia pero sí es verdad y hay que decirlo con la misma contundencia que en materia de seguridad

preocupantes hay algunos delitos preocupantes y sobre todo también y esto es novedoso hay nuevos tipos de delitos

están surgiendo en nuestra sociedad sobre los datos hay muchísimo de lo que se puede discutir recientemente hemos conocido datos parciales especialmente en relación

padece álava y el incremento especialmente también en algunos datos que han sido publicados en materia de delitos cometidos en domicilio utilizando la fuerza

de delito pero son asuntos que sin duda alguna provocan mucha preocupación entre los ciudadanos son datos que tienen una visión estadística pero tienen en el otro lado una percepción ciudadana y debemos trabajar en ambos para combatir también a ambos

absolutamente necesario decir en una tribuna como esta que la mejor herramienta para combatir

es precisamente las políticas sociales tener un alto nivel de cobertura social un alto nivel de prestaciones sociales un alto nivel de cobertura de las

para evitar problemas de desarraigo problemas con las personas más desfavorecidas contribuyen de forma esencial a evitar situaciones de inseguridad pero también es verdad

de todas las administraciones también es necesario reforzar y entender que hay elementos de preocupación en nuestras calles entre nuestros vecinos en materia de seguridad que no se resuelven exclusivamente mediante políticas sociales efectivas sino que requieren de una buena actuación policial de una buena coordinación en materia de seguridad por tanto hay una asignatura pendiente porque siempre la hay no es una cuestión que afecta ahora ahora hay una preocupación existe

que pueden preocupar en exceso algunos ciudadanos y responsables públicos seguramente sí especialmente cuando se tengan datos

datos que son más generales pero hay una cuestión de percepción

es muy importante resolver esa nueva tipología

tiene un papel importante en la resolución de una cuestión como esta

aún más debemos trabajar aún más reconociendo el trabajo de lo que se ha hecho hasta este momento diría incluso alguna cosa adicional no se trata con una iniciativa como esta en un momento de dificultad y

no se trata exclusivamente de pedir más de pedir más y de pedir más efectivos o más medios

no se trata de gastar más se trata de gastar mejor no se trata de tener más sino de organizar mejor

de los que se dispone y sobre todo se trata y se debe impulsar un aun mayor nivel de coordinación entre las administraciones

entre ayuntamientos diputaciones y gobierno vasco en materia de seguridad por tanto un mayor nivel de coordinación

y también las policías locales como alcalde también en euskadi quiero decir en nombre de una mayoría de alcaldes y alcaldesas vascos los alcaldes vascos queremos

queremos entendemos y valoramos el trabajo realizado

y también precisamente por eso reconocemos la necesidad de una mayor implicación y una mayor coordinación con las fuerzas de policía local en los diferentes

más no significa que no haya coordinación suficiente debemos hacer ese esfuerzo adicional para que esa coordinación permita por tanto que la percepción primero y luego la realidad de presencia policial en nuestras calles y la contrarrestación de todos los delitos que puedan surgir

en estos nuevos tiempos también tengan una respuesta efectiva insisto no se trata más se trata de gastar mejor se trata de organizarse mejor de coordinarse todavía más y de definir el modelo de policía

a las nuevas realidades me consta los esfuerzos de los diferentes gabinetes en el gobierno vasco en relación a este asunto siempre es necesario

a los miembros de los diferentes grupos en esta cámara que esos datos y esas percepciones existen siempre es un debate abierto y seguramente se puede contrarrestar un dato con otro

y quien tiene el sentimiento o inseguridad y ese sentimiento es un sentimiento absolutamente legítimo de muchos ciudadanos que contemplan por en ocasiones la

de algunos delitos en concreto generan una sensación que es necesario erradicar

sin duda alguna los recursos se trabajan adecuadamente sí pero con la misma contundencia se puede decir que debe ser mejorado y que debe incidirse todavía más especialmente en lo que tiene que ver

con las entidades locales con los municipios con los ayuntamientos

esa colaboración para que en nuestras calles haya más ertzaintza

a ese objetivo de permitir que la sensación de seguridad

en nuestras calles esta iniciativa señorías pretende por tanto reconocer el esfuerzo realizado por la ertzaintza pretende reconocer el esfuerzo de quienes

pretende incidir en la necesidad que hace manifiestamente evidente el hecho de que hay que potenciar ese esfuerzo de potenciar

en un momento en que está definido por nuevos tiempos para todo en lo político en lo social y también en asuntos relativos a la seguridad ciudadana nuevos tiempos requieren nuevas respuestas

pretende precisamente esto mismo quiero agradecer también la predisposición de otros dos grupos en la cámara el grupo socialista y el grupo nacionalista vasco para poder

y que precisamente trata de sumar a una posición general y trata también de contribuir a reforzar esos objetivos

una mejor seguridad ciudadana claro que sí además bajo coordinación de diferentes cuerpos

requiere esta iniciativa como cuerpo que tiene que tener ese liderazgo en coordinación

las policías locales como se piden en el primer punto de esta enmienda transada colaboración con ayuntamientos y diputaciones como se pide más adelante y coordinación con todas las diferentes policías locales en la elaboración de cuantos proyectos sean necesarios para mejorar e incidir en este punto

también activando la colaboración con la fiscalía y el tribunal superior de justicia del país vasco trabajando en coordinación con ellos en cuantas cuestiones puedan incidir en la mejora de nuestra seguridad ciudadana en primer lugar y en la prevención del delito

lugar la seguridad nos debe ocupar y también debe ocupar un papel predominante en nuestra acción política en el día a día en los ayuntamientos en las diputaciones
y en esta cámara como en esta ocasión parece se va a poner de manifiesto eskerrik asko muchas gracias eskerrik asko maroto jauna zuzenketak

eguerdi on guztioi coincidimos con la preocupación que se ha manifestado por el anterior portavoz en esta cámara

de delitos de cierta tipología en la comunidad autónoma noticia que ya ha sido recogida

y que ayer mismo tuvimos ocasión de conocer de primera mano en el informe

del país vasco los delitos de carácter violento como peleas robos con intimidación estafas robos en viviendas habitadas parece que repuntan

siguen incrementándose en nuestro entorno

entendemos que estos incrementos tienen una importante relación con las situaciones personales y familiares que se derivan de la crisis económica el progresivo empobrecimiento al que la crisis esta sumiendo importantes sectores de la sociedad

causa directa de esta situación las recetas que se están imponiendo por la derecha para salir de la crisis no favorecen precisamente una evolución positiva

consideramos que deben arbitrarse medidas de impulso de la economía y del empleo pues entendemos que esta es la mejor política preventiva del delito

sin embargo cuando se cometen delitos el estado de derecho debe funcionar y sus poderes deben responder de una manera eficiente

también tenemos que reseñar que la delincuencia sobre todo la organizada se adapta a los nuevos tiempos las innovaciones tecnológicas son aprovechadas también

generar nuevas tipologías de delito en euskadi trabajan con el objetivo de asegurar la integridad de las personas y bienes diferentes cuerpos policiales

es la más importante pero también es preciso reseñar la importante labor

y tampoco debemos olvidar el trabajo que desarrollan en nuestra comunidad la policía nacional y la guardia civil dependientes del ministerio del interior con este panorama

eficazmente con su labor las diferentes policías requieren de una imprescindible coordinación en este sentido nuestro grupo considera que es especialmente relevante

el objetivo que deben cumplir todos estos servicios públicos es incrementar la seguridad de personas y bienes

en esta materia no se trata de empezar de cero existe una experiencia producto del trabajo desarrollado durante muchos años que avala a nuestros cuerpos policiales euskadi

la actividad terrorista de eta como uno de los lugares más seguros de nuestro entorno

de mantener y mejorar esa imagen la victoria de la sociedad frente a eta debe servir para que esfuerzos que antes se dedicaban a contrarrestar la actividad terrorista hoy puedan ser dedicados a mejorar la seguridad de nuestra ciudadanía en resumen debemos consolidar y desarrollar las medidas aprobadas e implementar otras que nos conduzcan a la consecución de los objetivos nuestra policía

debe continuar en la línea de ser una policía cercana integral con más presencia territorial con más medios y más preparada con medios informáticos

que les permita desarrollar su trabajo en las mejores condiciones a pesar de que la organización del actual gobierno vasco

considero oportuno realizar en este momento una mención especial a este tipo de delitos

educación en las aulas prevención del delito y arresto y seguimiento de los delincuentes deben marcar una línea de actuación clara de nuestros poderes públicos al respecto

en consonancia con lo que he expuesto es por lo que nuestro grupo presentó una enmienda a la totalidad que recoge diferentes apartados y que se han fusionado

con aportaciones de los grupos nacionalista y popular en una enmienda transaccional en este sentido consideramos que la decisión del pleno de once de noviembre de dos mil diez fue una medida oportuna que hay que rectificar por ello nos congratulamos de que

hasta hoy la consejera de seguridad haya solicitado comparecer

que se han cometido en el ejercicio pasado pensamos que la puesta en marcha del plan de reorganización y

sin perjuicio de que se elaboren otros planes como el plan estratégico horizonte dos mil dieciséis que anunció la señora consejera en su comparecencia ante la comisión de seguridad yo he dicho en mi intervención que la coordinación con las policías locales es fundamental para la represión del delito y por ello queremos que se impulse un plan de coordinación con ellas

deben contar con los mejores medios y la formación adecuada para dispensar la mejor atención a la ciudadanía y por último consideramos que el acuerdo de contar con ocho mil agentes de la ertzaintza

a respecto hemos realizado una aproximación en la enmienda transaccional pero

zifrekin jolasten da en el texto original se asegura que en los tres primeros trimestres

de dos mil doce ha aumentado la criminalidad en nuestro territorio ayer precisamente tuvimos la oportunidad de escuchar al fiscal superior de la capv señor calparsoro que nos indicaba que en dos mil diez hubieron

mientras que al año siguiente en el dos mil once esta tasa había descendido a

es decir un tres coma cuarenta y siete por ciento menos

en el dos mil once con respecto al año anterior al dos mil diez y otro dato importante y es que todos estos delitos solamente terminan en el cuatro coma cincuenta y cuatro por ciento en sentencia condenatoria una eficacia policial y penal más bien

cuestionado sobre los datos referentes al dos mil doce el fiscal superior asumió que aunque todavía no eran definitivos sí parecía que había un ascenso en los casos

lo que descendió en el dos mil once vuelve a crecer ahora en el dos mil doce según los datos que hasta ahora tenemos a nuestra disposición no tener en cuenta

esto nos puede conducir a conclusiones erróneas egia da

errentagarriagoa da inklusioan inbertitzea delituaren errepresioan baino en vez de ir a la raíz del problema

generadas por un sistema económico profundamente injusto la solución que se nos propone

algo que ya veíamos en el propio texto original y en las enmiendas que se le habían planteado en la propuesta del pp se podía leer presencia policial en la calle enmienda del pse se leía presencia territorial y en la calle en la del pnv presencia cercana de la ertzaintza en los diferentes entornos geográficos que es la que he podido encontrar en la

pero no llegamos a entender por qué se pretende equiparar presencia con efectividad vemos policías en la calle están en sus coches hacen rondas pero no parece eficaz mejoran los ratios de prevención de delito

de inseguridad que parece ser tiene

por supuesto desde eh bildu preferimos una policía presente que una policía acantonada y acuartelada como son algunos de los modelos que vemos pero consideramos que además de esta mera presencia es necesario algo más abogamos por una policía

en el día a día comunitario en la línea de la labor

la policía local ese es nuestro modelo de policía de proximidad quiero detenerme un minuto en un elemento que aparecía en la primera propuesta redactada por el pp

de cuál es el ámbito de interpretación

un concepto que ahora parece retirado pero que resulta hiriente saben que la figura penal de reincidencia solo opera en la estimación de la pena tras la celebración del juicio es una circunstancia

aquí se plantea que opere como un estigma previo a modo de san benito

elemento de detección de presuntos autores de delitos eso es una auténtica aberración la perversión de una figura penal con un tic autoritario

del infractor de resocializarse su futura presunción de inocencia con este elemento se pretende castigar personalidades o formas de ser creándose una casta de personas antisociales

que suena a la restauración de aquellas leyes de vagos y maleantes

y que debían por ello estar sometidos a control social pentsatzen dugu ertzaintzak eredu berri baten arabera funtzionatu behar duela

urtean sin embargo los datos que recibe el partido popular

la justificación de su proposición no de ley si bien es cierto que luego el señor maroto no los ha reproducido

son muy parciales en algún caso e incorrectos en otros y cuando se afirma de esta manera que han aumentado los

sin duda deben referirse a los datos del primer trimestre del dos mil doce pero ya están los datos correspondientes

del partido popular tiene los datos correspondientes al año dos mil doce y efectivamente en el primer trimestre del año dos mil doce se produjo un incremento de un cincuenta por ciento

dolosos o asesinatos en la comunidad autónoma del país vasco efectivamente se pasó de dos a tres hubo un incremento del cincuenta por ciento pero la comparación del año completo dos mil doce respecto al dos mil once da un incremento cero en esos delitos por ejemplo si ustedes basan

entre otros en ese dos datos dan y uno de ellos es eso

ese aspecto incremento alguno tampoco es cierta la afirmación que se realiza de que euskadi encabeza la lista de las autonomías en el aumento de la delincuencia no es cierto en los datos del año dos mil doce respecto al dos mil once

forman parte también de ese binomio entre seguridad real seguridad percibida que efectivamente

está reconocido mundialmente y es un tema objeto de preocupación y de debate para los responsables públicos pero

es un tema de preocupación para los responsables públicos pero en los que también tenemos una parte importante de responsabilidad en la generación

muchas veces con nuestras declaraciones con nuestras afirmaciones exageradas a veces intentando incluso hurgar en la lucha política o sacar

de determinados debates hacemos afirmaciones absolutas exageradas que vienen a aumentar la sensación de inseguridad percibida o la inseguridad percibida cuando la inseguridad real no se corresponde por lo tanto no es cierta esa afirmación de que euskadi encabeza la lista de las autonomías en el ámbito de la delincuencia y no es bueno que la traslademos a los ciudadanos por encima de la comunidad autónoma vasca en el año dos mil doce se encuentran navarra y asturias

y en euskadi por ejemplo nos encontramos con unas tasas de infracciones penales de cuarenta y dos por mil habitantes por debajo de la media del estado que se encuentra en cuarenta y ocho

muy por debajo de comunidades como baleares con un setenta y siete madrid

la comunidad valenciana cincuenta y cuatro y cataluña con un cincuenta y nueve coma ocho tal y como afirmaba ayer el

euskadi tiene una baja tasa de criminalidad efectivamente como él también decía eso no debe hacer que nos durmamos en los laureles y

el objetivo de nuestras instituciones y creo que es el que persiguen los firmantes de la enmienda transada ha de ser siempre la mejora de los servicios públicos en general y de la seguridad ciudadana en particular en este sentido como también se ha manifestado

las medidas de impulso del empleo las políticas públicas de lucha contra la exclusión social

son la mejor receta para combatir el delito o para mejorar la seguridad ciudadana probablemente

por eso esta comunidad autónoma ofrece mejores ratios respecto a otras comunidades del estado y está en cabeza de todas ellas porque el sistema de protección social

han sido superiores a la media y esa es la prueba evidente de que eso es importante también para la prevención del delito y ese efectivamente es el objetivo la prevención de la mejora de los servicios públicos en general y el de la seguridad ciudadana en particular

actualmente digo actualmente y al igual que lo ha venido siendo hasta ahora lo ha sido antes de que se celebrase el debate de hoy y lo seguirá siendo en el futuro

en constante evolución y mejora dando respuesta a la realidad delictiva de cada momento la consejera ya en su comparecencia en comisión para presentar las líneas de actuación durante la legislatura afirmaba que son misiones básicas de las políticas de seguridad garantizar el libre ejercicio de derechos y libertades proteger a las personas y sus bienes

y anunciaba los tres pilares básicos en los que se sustentan las políticas que impulsa este gobierno mayor cercanía y proximidad a la ciudadanía que requiere y valora los servicios de seguridad un uso más eficaz y eficiente de los recursos humanos

y estos tres pilares que marcaba la consejera de seguridad se encuentran perfectamente recogidos en los siete puntos de la enmienda transaccional

el grupo nacionalistas vascos junto con los grupos parlamentarios socialista y popular una enmienda que no pretende más que continuar en el camino de la mejora continua

reforzando la presencia y la cercanía de los agentes tanto en zonas urbanas como rurales con una planificación estratégica

dos mil dieciséis con tres ejes básicos como son el impulso a la seguridad ciudadana el impulso a la información y al investigación y el impulso a un nuevo modelo de gestión y se hará

consejera como uno de sus retos fundamentales de la legislatura desde la mayor colaboración con los diferentes agentes tanto públicos como privados ayuntamientos policías locales y también ayuntamientos que no tienen policía local pero tienen necesidades de seguridad

presidenta de manera muy breve para decir que votaremos a favor de la transaccional que han firmado el grupo popular el grupo nacionalistas vascos y grupo socialistas vascos

alarmistas que no aportan nada bueno creo que afortunadamente se ha llegado a una transaccional que efectivamente no crea y que apunta a lo que debe hacerse para mejorar la seguridad de los ciudadanos creo que efectivamente propone actuaciones y decisiones perfectamente razonables muchas de las cuales ya se están llevando acabo en los últimos tiempos y que desde luego y posiblemente esto sea una de las cosas más

deben ser acompañadas por una mejora continua de los servicios públicos una mejora continua de la prevención y una mejora continua de la red de protección social creo que esto último en definitiva es lo más importante en todo caso ya digo votaremos a favor de esta transaccional que creo no crea alarma

y entendibles por una mayoría de ciudadanos nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko txandan sartuaz euskal talde popularreko

presidenta en primer lugar querría aclarar creo que

que los datos existentes en la justificación de esta proposición no de ley

si bien es cierto que a la fecha de la confección de esta propuesta también es verdad que hay nuevos datos que van en diferentes direcciones

hemos también contrastado la existencia de datos especialmente en el territorio histórico de álava y en la capital en vitoria que apuntan a algunas cuestiones que deben ser reforzadas en el ánimo constructivo lo digo en el ánimo de contribuir a esa eficacia de la coordinación entre ambas fuerzas la policía local y la ertzaintza

la coordinación entre la policía local y la ertzaintza cuál es el problema de reforzar la acción en nuestras calles para ser más efectivos no he entendido de su intervención cuál es el problema he entendido porque lo hemos dicho todos no es ninguna novedad que las políticas sociales

de que la inclusión y creo que le parafraseo que la inclusión está precisamente dirigida a incorporar

está muy bien y eso es así y es efectivo pero no es alarmista decir que además existen

y lo sufren para comprobarlo pero esto es una evidencia y que la política social no es exclusivamente

posibilidad usted antepone presencia a efectividad y yo creo que es absolutamente complementario la efectividad

se contrasta a través de los datos pero la presencia de la ertzaintza y de la policía local físicamente como en muchos municipios de nuestro entorno

en otras capitales y municipios en el día a día transcurriendo atendiendo siendo conocidos incluso personalmente por los vecinos de cada barrio

también contribuye al otro efecto que es el efecto precisamente de generar una sensación de seguridad ciudadana que va precisamente en contra del alarmismo al que alguno hacía referencia yo he dicho en esta tribuna y lo repito ahora

y estamos a favor de defender a este cuerpo y además hacerlo en una mayor coordinación con las policías locales yo me pregunto

y usted también o ustedes también porque sería una auténtica novedad solo escucharles aquí en esta tribuna decir lo contrario hoy sería también una noticia también usted está a favor de la ertzaintza porque es muy difícil de explicar que uno venga a defender que se dice y que se piensa hace falta contribuir a la seguridad ciudadana y que hace falta contribuir a la efectividad de la seguridad ciudadana cuando después no se es capaz de decir contundentemente que se está a favor de quién tiene que ejercer esa labor que es en este caso

tiene la oportunidad no sé si le dará tiempo porque suelen requerir de algún tiempo adicional

que pretende decir mucho en alguna ocasión y que después cuando se dicen pero tiene la oportunidad para decirlo sería sin duda un paso importante que hoy usted y su grupo dijesen que además de estar a favor de la seguridad ciudadana también están a favor

además de las policías locales que es de lo que se trata en esta moción en el día de hoy de reforzar esa acción de reforzar esa coordinación

a un objetivo que no pretende otra cosa que la seguridad se extienda

que la seguridad se perciba y que además algunas cuestiones relevantes como incido en alguna ocasión y que además han hecho referencia otros portavoces y los diferentes medios de comunicación si hay nuevas formas de cometer delitos

hace falta un nuevo sistema o una nueva metodología y eso es fundamental

pero creo que deben hacer también esa reflexión quienes no van a votar

y también explicar las razones por las que no yo creo que hay

bastantes más razones en lo que he dicho de lo que

salga aquí salga aquí ahora después y diga claramente estoy con la ertzaintza y con el cometido que la ertzaintza hace

en la coordinación con las otras fuerzas de policía municipal pero diga claramente porque no se ha oído en otras ocasiones por parte de lo que usted representa aquí

estoy con la ertzaintza se lo van a agradecer muchos agentes muchas familias y desde luego todos los demás

lo que le puedo asegurar es que nuestra enmienda de totalidad y en la enmienda

lo único que nos preocupa es la seguridad de las personas y de lo bienes

porque creemos que es una obligación de los poderes públicos hacer sentir a toda la ciudadanía la decisión firme de ellos

de asegurarles sus bienes como decía y la integridad de ellos mismos como personas sinceramente creo que su intervención ha sido causa de un prejuicio

rápida de la iniciativa inicial pero sinceramente creo que no ha tenido en cuenta para nada

donde no se recoge para nada lo que usted decía de incremento policial

sino simplemente se pretende continuar en la vía

de mejora de la seguridad de los ciudadanos y de las ciudadanas ese es el único
objetivo que tiene esta enmienda de transacción nada más muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna eh bilduren

que ven claro que hay que actuar de forma preventiva sin embargo es curioso ver que en el texto de la transaccional que nos proponen

a dónde están las causas del problema dónde está el origen del problema como es una situación de crisis económica y social la que genera la que genera

y de esto absolutamente hacen dejación en los siete puntos en los cuales tienen redactado el texto de la transaccional

quiero mencionar un punto que he visto en la transaccional que me parece de difícil equilibrio ya que incorporan el

con el anunciado plan estratégico horizonte dos mil dieciséis que

la consejería de seguridad del gobierno actual un plan este último apelaba a la marca de un nuevo modelo policial pero que ahora vemos vinculado a ese plan anterior del gobierno

lo cual nos hace pensar que este nuevo modelo policial que se nos anuncia por parte del nuevo gobierno va a tener ciertamente poco recorrido

eskerrik asko presidente andrea señor maroto usted decía que

los datos que incorporaban eran a la fecha de la presentación de la proposición

tan gruesas yo decía que no se corresponden con las realidades en todo caso a la misma fecha

es el documento del ministerio de interior del que ustedes sacaron los datos

aumento del cincuenta por ciento en homicidios dolosos y asesinatos

y estos de la misma fecha señor maroto son del mismo origen ministerio del interior informe anual dos mil doce respecto al dos mil once en el que el incremento

incremento cero por lo tanto mi objetivo cuando yo hacía esa referencia en mi primera intervención no era

que por cierto de la lectura de su proposición no de ley al inicio es lo que me salía y pensando en que

la sensación de inseguridad percibida a aumentar la alarma social es cierto que luego

alrededor de la enmienda transada pues todo eso hemos conseguido llevarlo a sus justos términos

la responsabilidad que tenemos los responsables políticos los responsables institucionales

para que la seguridad percibida sea de una manera o de otra y que debemos actuar con responsabilidad y sin alarmismos para no crear una sensación que no se corresponde con la realidad el señor arzuaga

al que llamaba nuestra enmienda transaccional yo sinceramente no sé de dónde

no se hace referencia todo lo contrario a ningún incremento policial y en ese sentido yo estoy de acuerdo con usted que el discurso alarmista es pernicioso

de nuestros ciudadanos pero tan pernicioso como el discurso alarmista es el discurso seráfico de que aquí con mejorar la red de servicios sociales con hacer una sociedad más justa vamos a borrar con la delincuencia vamos a acabar con la maldad en el ser humano

de que es necesario una son tan conscientes que luego de que es necesario un servicio de seguridad de una policía en nuestra sociedad que acto seguido

policía de proximidad exactamente la misma que es la que propone

en sus inicios en su objetivo fundacional la que anunciaba

recuperar esa idea de policía de proximidad de policía cercana a la ciudadanía

impedida ha estado por la existencia

de una banda terrorista no solo de una banda terrorista que asesinaba

asesinatos que señalaba o que prendía fuego como ha sucedido en más de una ocasión

sufren y muy descarnadamente las consecuencias de esas acciones por lo tanto bienvenidos a la idea de la necesidad de una policía y de una policía de proximidad

lo que demuestra la enmienda transada es que los tres grupos que la firmamos estamos en línea en sintonía total con la propuesta del gobierno vasco

en su comparecencia en las que se reafirmaban y yo quiero hacerlo hoy aquí también la mejora continua

la planificación estratégica el reforzamiento de las señas de identidad que comentábamos las señas de identidad fundamentales recuperación de una policía de proximidad una policía del pueblo con el pueblo y para el pueblo y desde la coordinación con todas las instituciones y

pedida la comparecencia para hablar de los datos relativos a la seguridad en el año anterior y se hace porque en la legislatura pasada así lo aprobó esta cámara a iniciativas

gracias presidenta hablamos de las aportaciones financieras subordinadas emitidas por fagor y eroski y comercializadas por

hablamos de miles de ciudadanos vascos afectados y perjudicados y hablamos y seguramente sea lo más importante de posibles soluciones a esto que nosotros consideramos un fraude generalizado y cometido y que han terminado pagando como digo ciudadanos vascos que lo que esperan es que los representantes políticos seamos capaces de dar con la mejor solución posible

sociales las sociedades cooperativas para financiar el crecimiento y nuevas inversiones que permitan adquirir

aceptar socios colaboradores financieros emitir aportaciones de capital voluntario dirigidas a los socios emitir aportaciones financieras

las aportaciones financieras subordinadas no son participación social sino títulos de deuda perpetua y subordinada su duración es perpetua tienen carácter de titulo o valor

como en cualquier inversión de deuda corporativa existe en su caso el riesgo de impago de las empresas emisoras se llaman subordinadas porque a efectos de prelación de créditos se sitúan detrás de los acreedores comunes o por créditos ordinarios

han sido también entidades colocadoras la caixa bbk caja laboral banco baskonia banco sabadell

se trata de un producto financiero de alto riesgo de duración perpetua y cuya liquidez más bien escasa o nula depende del mercado el problema fundamental más allá de que podamos analizar las características de este producto y si por ejemplo

es que toda la información de la que ahora disponen ustedes y dispone un servidor sobre las características de este producto financiero fue

omitida parcialmente contada manipulada o corregida

de la entidad financiera es decir a los que decidieron adquirir este producto aconsejados obviamente por trabajadores de la entidad o entidades financieras se trata por tanto de un producto comercializado en nuestra opinión de manera

colocado a personas con las que existía un alto grado de confianza y quienes por tanto se dejaron asesorar por quien se suponía podían confiar siendo

el fraude el problema es que haya habido entidades financieras que nos hayan transmitido a nosotros

que a sus clientes el problema es que muchísimos de ellos miles la mayoría de ellos ahorradores nunca inversores fueron engañados y estafados no se les informó adecuadamente de que se encontraban ante un producto de alto riesgo con escasa o nula liquidez y perpetuo según los estudios con los que contamos

que estos productos se colocaron inicialmente ni siquiera se conocían por lo que es impensable que se produjera

marea de solicitudes motu propio por un producto que era desconocido

y convencidos de que este producto les interesaba y les convenía transmitiéndoles como digo una información sesgada incompleta o manipulada técnicos en la materia así lo confirman de los folletos o trípticos entregados

que estos productos fueran de alto riesgo tuvieran liquidez nula o limitada y fueran de duración perpetua no se podía saber estamos hablando de miles de ciudadanos

justa y estamos hablando en nuestra opinión de responsables que llevaron a cabo actuaciones muy poco honestas muy poco profesionales y muy engañosas

por esta estafa hemos asistido y participado en charlas sobre la materia hemos preguntado también oralmente al gobierno

solicitado comparecencias parlamentarias y hoy defendemos esta iniciativa que no tiene otro propósito

a miles de ciudadanos estafados este es el propósito último de esta iniciativa dar una solución a miles de ciudadanos que a día de hoy se sienten estafados

esta iniciativa en la que por un lado proponíamos que este parlamento instara al banco de españa como organismo regulador y a caja laboral y al resto de entidades financieras

a que adopten las medidas necesarias para que se reembolse de forma inmediata

a aquellos consumidores con un perfil de riesgo conservador es decir sin experiencia inversora previa sin cultura financiera y sin formación suficiente a todos aquellos que así lo deseen y por otro lado proponíamos instar kontsumobide a intervenir de oficio en el conflicto suscitado entre caja laboral y otras entidades financieras y

durante los últimos años a fin de establecer si la información ofrecida por caja laboral pero también por el resto de entidades financieras fue lo suficientemente completa y clara si no pudo inducir a error y si no puede tildarse

efectivamente a partir de esta iniciativa original se han presentado distintas enmiendas de totalidad algunas de ellas recogen asuntos ciertamente

más interesante nos ha parecido ha sido la enmienda del grupo socialista creo que plantea asuntos que nosotros compartimos asuntos que nos parecen

la enmienda del grupo socialista que mejora que mejora en algunos de sus puntos la propuesta original en fin no hemos hecho

con el señor prieto de pactar una transaccional porque había ya pactada una transaccional entre el grupo nacionalistas vascos y eh bildu que obviamente tendrá el apoyo de la mayoría de los parlamentarios y saldrá aprobada en todo caso como digo el objetivo de esta iniciativa

de buscar la mejor solución posible para solventar los problemas que están padeciendo a día de hoy miles y miles de ciudadanos vascos no se sabe la cifra

señora presidenta señoras y señores hoy tratamos en particular de un producto utilizado para financiar

que a su vez es un producto de ahorro de decenas de miles de vascos y vascas

a conocer como una práctica abusiva de algunas entidades financieras que ponen en el mercado productos que no tienen el objeto

al ahorro sobre todo de los pequeños ahorradores sino más bien el de especular y el de introducir productos que si en su origen pueden tener unas características

sistemas de ahorro sobre todo de esas personas con menos recursos terminan convirtiéndose en productos tóxicos altamente tóxicos

se trata de saber hoy si este parlamento quiere de verdad buscar soluciones en el ámbito de sus competencias y en el ámbito de la comunidad autónoma vasca

que es lo que una mayoría puede estar tratando de pretender en esta cámara

esta aseveración antes de seguir lo que son los elementos más particulares o concretos de lo que nos trae aquí hoy a iniciativa

quiero hacer una puntualización que no me parece menor y es que hoy esta cámara no está haciendo un juicio de valor sobre eroski sobre fagor sobre caja laboral

de lo que eso significa en la economía de lo que significa en el empleo en la actividad a la que se dedican la capacidad de posicionar

en el mundo no estamos hablando de nada de eso sino que estamos hablando muy concreto muy particular de un producto financiero y de ahorro que está creando unos problemas a muchos ciudadanos y ciudadanas y que precisamente la mejor forma de ayudar a eroski a fagor a caja laboral al grupo mondragón a que tengan

en sus actividades es corrigiendo algunas cosas que no solamente a ellos

entidades financieras colocadoras se le han ido de las manos porque hay que decir que estas subordinadas

que ha estado participado que ha estado colocado por numerosas entidades financieras donde la suma de todas ellas sería mucho mayor que la que pueda estar soportando caja laboral por lo tanto

los socialistas hacemos a la propuesta del señor maneiro una propuesta que compartimos mucho porque está en sintonía

el haber podido trabajar después de su iniciativa nos ha permitido quizás apurar algunas cosas más y por eso hemos planteado

nueve propuestas nueve medidas para que este parlamento diga por un lado que repudia aquellos abusos que se están dando en este tipo de situaciones en segundo lugar propone que haya un asesoramiento

de todo tipo de productos financieros tóxicos por parte del gobierno vasco porque además este es un producto que nace de una ley que aunque la ley no esté pensada para causar el daño que está causando sin embargo

en tercer lugar planteamos que el gobierno vasco con ayudas atienda a los afectados para poder ejercer acciones legales en cuarto lugar queremos que desde el gobierno vasco se haga un censo de afectados por todos los productos financieros

a defender a los afectados en el ámbito de sus competencias que las tiene y muchas para que se pueda ayudar a resolver este problema en sexto lugar

un elemento de diferencia sustancial con la propuesta mayoritaria que se ha presentado como transaccional

del cien por ciento del capital invertido a aquellos que están afectados de forma fraudulenta

por la asociación de usuarios de cajas bancos y seguros en séptimo lugar planteamos una colaboración de las entidades financieras e instituciones para desarrollar controles que impiden esto es decir que haya

con las instituciones financieras para establecer mecanismos que impidan que esto pueda seguir produciéndose en octavo lugar planteamos derogar

este problema aunque no estuviera pensado para eso por lo menos sí nos gustaría que se estudiara cuál es la utilidad o bajo qué idea habría que precisar ese artículo que permite este sistema de financiación y en noveno lugar planteamos que se cree un sistema de mediación que no es el que se plantea por la mayoría sino que es una mediación y arbitraje que hay que proponerla

esta cámara y que tiene que ser en el consenso de los grupos políticos cuando veamos que realmente se apuesta por una mediación que va a ser eficaz y que puede servir para los fines

a esta propuesta y frente a la propuesta también de upyd como

de la iniciativa hay una enmienda transaccional del partido nacionalista vasco

pero que no tiene esa mayoría en mi opinión una clara defensa de los afectados porque evita profundizar en medidas concretas la señora

que es una propuesta que sobrevuela por el problema pero que no aterriza en ningún momento porque no sé si se ha pretendido hacer un quiebro que ustedes tendrán que explicar mejor

ha estado usted muy expeditiva daba la impresión de que más que querer llegar a este

pueda hacer una intervención con más detalle para saber exactamente a qué juegan ustedes si se colocan del lado de los afectados con la rotundidad y contundencia que ustedes quieren

ayudan simplemente al gobierno a hacer un pequeño trámite en esta cámara y salir con poco fundamento de ella por lo tanto es una propuesta que trata de evitar que este parlamento se posicione sobre algo mucho más concreto que está ofertado por dos grupos en esta cámara y tampoco sería mal repensara su postura y que quizás tratara de buscar un mayor consenso y una mayor profundización que como digo usted la ha esquivado en todo momento porque no ha aparecido por ningún lado

con más profundidad para intentar este acuerdo lo han hecho rápidamente con el partido nacionalista vasco y esto huele a otra cosa que igual hay que explicarla

señoras y señores esta semana ha habido en esta cámara

comparecencias de los afectados y también de la asociación de

esta semana los afectados en esta cámara han dicho

un producto que estaba destinado a un determinado perfil inversor que no cumplíamos muchos de nosotros como así lo dice la publicidad del producto pero que aún así

se les buscaba que se les llamaba y que se les llegó a ir casa por casa en algunos lugares para vender este producto los afectados nos han dicho que aceptaron en muchos casos este producto porque tenían confianza

y porque a su vez tenía también un desconocimiento de qué es lo que compraban estamos hablando de un producto que cuando se vendía y cuando se explicaba lo que se vendía

pero en muchos a tenor de las propias manifestaciones de los afectados lo que se explicaba es que tenía

una inmediata recuperación del dinero invertido y que además tenía una plena seguridad en el mantenimiento de su valor esto se decía hace un tiempo ahora con lo que nos encontramos es que ese mismo producto tiene tres características también

con una reducción importante por los altos costes del derecho de custodia la imposibilidad de recuperar la inversión como bien sabe también el partido nacionalista vasco y la depreciación del activo

es también evidente eso teníamos eso nos encontramos y además hay miles y miles de afectados

que este producto solo debiera ser para personas con conocimiento inversor para personas con experiencia a la hora de tomar riesgos y que estuvieran habituadas a este tipo de productos y para personas con una situación económica buena

y de alto riesgo sin embargo con estos datos y con estas consideraciones este parlamento lo que tiene que hacer es pronunciarse y se tiene que pronunciar con una cierta rotundidad y claridad sobre

que viven de su trabajo que son los que tienen ahora este producto

hecho ha sido conseguir poco a poco algunos modestos ahorros que han confiado en la idoneidad de lo que se les vendía y que ahora no tienen ni beneficios ni ahorros

en una situación económica tan difícil y tan dura a los problemas que tienen ellos y sus familias hay más porque por parte de los afectados hay una generosidad y unas ganas de solución que lo han demostrado esta semana en las comparecencias y que parece que no han llegado a sensibilizar lo suficiente a algunos grupos de esta cámara y muy especialmente

hablaban de que podría haber una solución devolviendo parte de lo invertido

una tercera que se podía conjugar con un prestamo una cuarta que se podía cambiar por productos de ahorro fiables de otro tipo distintos más sanos

incluso llegaron a plantear que se podía cambiar dentro del grupo mondragón por productos de los que se comercializan por lo tanto
cuando se plantea propuestas desde los afectados prieto jauna amaitzen joan

cuando se está buscando por parte de los afectados soluciones y las están poniendo encima de la mesa me parece que es bastante duro este parlamento no tenga la sensibilidad de aproximarse mucho más a sus problemas fíjense ustedes hasta el fiscal superior del país vasco ayer decía que

nulos los contratos con devolución de la cantidad depositada aplicando la legislación y la jurisprudencia europea sobre consumo por lo tanto

los que no tienen la obligación de resolver problemas de los ciudadanos van a ir por delante de lo que va la política y la mayoría en este parlamento termino señoras y señores son las leyes las que salen de los parlamentos son las leyes las que deben garantizar

son las leyes las que regulan las actividades de la sociedad son las leyes las que deben de garantizar el interés público y la transparencia son las leyes las que deben preveer para evitar los abusos y los fraudes por eso cuando se detecta falta

abusos y fraudes hay que reunirse en los parlamentos revisar las leyes proteger a los afectados y tomar medidas

participaciones que se emiten en este caso por dos cooperativas vascas concretamente guipuzcoanas fagor y eroski

su expansión y su creación de empleo estas aportaciones financieras las pueden adquirir cualquier ciudadano a cambio de un interés pactado y explicitado desde el principio en concreto eroski efectuó cuatro emisiones los años dos mil dos dos mil tres dos mil cuatro y dos mil siete por un montante de seiscientos sesenta millónes de euros

ochocientos cuarenta y cinco millónes de euros los intereses se mostraban claramente en la publicidad oscilaban entre el ocho por ciento para los primeros seis meses de la primera y el seis coma setenta y cinco para la última y a partir de ahí se ha movido en una oferta de euribor más tres coma cinco

hasta aquí todo parece correcto y en términos generales para los intereses en que se ha movido el dinero en los últimos diez años podía resultar interesante para renta fija

está más bajo y por tanto su rentabilidad evidentemente ha bajado así mismo

sino por una letra de la ley de cooperativas del año dos mil estas aportaciones subordinadas lo son a perpetuidad hasta la extinción de los hasta julio de dos mil doce estos bonos se podían

un mercado lento y no había grandes movimientos a partir de julio de dos mil doce la cnmv no eroski ni fagor la propia cnmv exige el paso al mercado send el mercado send es electrónico

muy similar al de negociación de acciones en bolsa al hilo del escándalo de las preferentes de diversos bancos españoles que por cierto al poco fueron intervenidos por el banco de españa algunas personas se preocuparon por la situación de sus bonos de las cooperativas vascas

y al observar que su valor en el mercado send había descendido notablemente hasta el cuarenta por ciento lógicamente se preocuparon

intereses que han desembocado en el debate que hoy nos concita se crearon asociaciones de afectados hubo protestas cartas solicitudes a la administración de amparo y la proposición no de ley del señor maneiro

de salud y consumo así como una pregunta al lehendakari que se sustanció el pasado viernes contestada por el señor darpón independientemente de la preocupación

y alguna con razonable contenido vuelvo a insistir que las subordinadas no son preferentes

hasta la extinción de la sociedad y lo digo porque se ha venido insistentemente hablando de preferentes

que siempre son bancos también lo sea y considerando que precisamente se emitían para solventar su propio insolvencia resultaban un bucle

y no estamos en el caso dicho esto y ante la relevancia que adquiere para estos asuntos la comercialización del producto financiero

advertir un intento intencionado de dirigir la responsabilidad de la comercialización a una entidad bancaria concreta a caja laboral

en ambos casos las entidades bancarias responsables principales de las ventas de los bonos fueron bbva y santander qué interés hay en cargar las tintas de la responsabilidad comercializadora en una sola entidad bancaria

las posibles desinformaciones se pudieron haber producido en la comercialización del producto

yo he hecho algo de trabajo y sé que por utilizar el caso de la entidad caja laboral el total de los clientes con subordinadas es de doce mil doscientos con un saldo medio de dieciséis mil doscientos euros

corresponden a clientes conocedores del producto y con experiencia inversora bien porque son personas jurídicas

con experiencia previa en inversiones de este tipo también sé que un veintinueve coma dos por ciento

no están riesgo patrimonial al haber diversificado su inversión con un rigor

del resto del veintiuno por ciento sé que ochocientos hicieron más que una compra lo que les hace potenciales conocedores del producto

tiene compras por menos de diez mil euros y de los restantes

pero sí hay efectivamente hay algunos que tienen aportaciones que suponen más del veinte por ciento de su patrimonio al menos del depositado en caja laboral también de mis conocimientos sé

han cobrado hasta el momento sus intereses puntualmente cada treinta y uno de enero que los compradores de fagor dos mil cuatro han cobrado el cincuenta y seis por ciento de lo invertido

y los adquirientes del dos mil seis el cuarenta y uno por ciento que de los de fagor

hasta aquí datos reales contrastables ciertos y objetivos

difícilmente verificable y que en la mayor parte de los casos queda en el fangoso terreno de la sospecha matriz de muchas injusticias

y varios afectados resultando de tales indagaciones nada que yo crea objetivo

con los diferentes interlocutores si el pasado lunes el responsable estatal de adicae señalaba en este parlamento que la media de compras de los clientes de bonos era de cuarenta mil euros e inmediatamente la responsable en euskadi le decía que era de doce mil

sí podría ir concluyendo que me consta que una parte relevante de los adquirientes de bonos eran suficientemente conocedores de lo que estaban comprando al tiempo de que no tengo duda de que otros compradores adquirieron los bonos sin saber lo que

o por su confianza en el banco comercializador en el director de la sucursal bancaria donde tienen depositado los ahorros

y en el intento que también nos están exigiendo de buscar soluciones hemos entendido tanto el grupo eh bildu como el grupo nacionalistas vascos

la organización del propio gobierno vasco dedicada a la regulación y al control de las prácticas de consumo en euskadi para que analice con más profundidad que lo que ha podido hacer este humilde parlamentario y en su caso pueda arbitrar

lo hacemos porque aunque pensamos que en general la práctica parece que se ha hecho con cierta corrección

puede que existan casos concretos a estudiar y solucionar

flojo pero hemos intentado mejorar lo que el partido popular y el partido socialista hicieron en madrid al pactar un sistema de mediación del banco de españa

y arbitre soluciones gustatuko litzaidake

la exclusiva responsabilidad de la comercialización y de supuestas prácticas bancarias incorrectas a una sola entidad que en ninguno de los casos llegó a comercializar el cuarenta por ciento a veces la razón que alguien pueda tener queda relegada

cuando se utilizan argumentos subjetivos y sesgados trasladando sospechas y no certezas en este caso a empresas vascas solventes y prestigiosas todo se pervierte cuando se pretende buscar la verdad utilizando falsas verdades

muchas gracias señora presidenta yo creo que todos nos hemos reunido con todo el mundo y todos hemos escuchado a todo el mundo y cada uno habrá sacado las conclusiones que le habrá parecido pertinentes pero yo sí quiero matizar algunas cosas porque

cuando menos me han sorprendido un poco digo un poco porque todo el mundo dice que las aportaciones no son las preferentes de los bancos

y entonces uno se queda todavía más perplejo porque si no son por qué se hace ese discurso pero bueno yo por recordar

que son emisiones de dos empresas en fin yo a los señores de bildu estamos hablando de fagor y de eroski no hablamos de la gran banca internacional que ha hecho no sé qué a efectos de engañar a la gente para autofinanciarse porque es que ustedes han salido aquí a hacer un discurso

no sabemos de qué hablamos sí hablamos de un problema de unos bonos que emitieron en su día eroski y fagor

y evidentemente estamos hablando de un problema que afecta a dos empresas vascas

eroski y fagor y por lo menos habría que exigir a todos los grupos por la relevancia que tiene

con cierta seriedad en vez de venir aquí a hacer la demagogia de la gran banca y de las preferentes

y cuando décimos el señor maneiro ha explicado perfectamente la diferencia entre una y otra

y otras solo se les ha olvidado a casi todos una cosa que es que en estas aportaciones

en la propia ley que por lo visto ahora algunos dicen que hay que cambiar y en su momento nadie se planteó eso y por lo tanto de las mayores personas que tienen

socios cooperativistas de estas cooperativas que es deuda perpetua sí pero no no pero sí porque claro es perpetua

las entidades emisoras decidan que lo sean porque tienen la posibilidad de amortizarla antes dentro del plazo de los cinco años siguientes a la emisión si

del que existe en el mercado para autofinanciarse pues parece que lo lógico es pedir créditos más baratos que el ocho por ciento como se pagaba en un principio por estas aportaciones

entonces evidentemente las empresas en este caso eroski y fagor se reservan el derecho de amortizar anticipadamente si encuentran una financiación mejor y digo que es

y aquí es donde opera y donde juega la palabra subordinada que quiere decir que son los últimos en cobrar si cierra una empresa

y evidentemente deja de ser perpetua si el que ha comprado la aportación la vende

y yo conozco de algún caso de alguien que compró vendió y lo volvió a comprar

lo que el señor maneiro dice una colocación fraudulenta pero claro cuando alguien la compra por dos veces después de haberla vendido antes

en algunos casos determinados nos dicen

upyd que es contradictoria y es contradictoria con la enmienda del partido socialista porque si ambos piden que el gobierno vasco

digamos que es incompatible con pedir que los bancos devuelvan el dinero porque si lo devuelven qué conflicto hay que resolver

es decir si además de decir que hay que devolverles el cien por ciento del capital invertido además se quedan con los intereses cobrados hasta ahora que en fin lo primero tiempos eran del ocho por ciento

por ciento como se ha explicado aquí en alguno ya ha amortizado teóricamente el cuarenta por ciento del capital invertido pues no es mal negocio no es mal negocio para casi nadie pero claro por qué tiene que devolverlo los bancos si lo beneficiarios son eroski y fagor que es lo que yo no entiendo del psoe y de upyd es decir oiga si alguien tiene que devolver no serán los bancos

por lo tanto lo lógico y lo coherente con su propuesta inicial sería

devuelvan ese dinero si ustedes consideran que se ha obtenido fraudulentamente y yo no le voy a decir ni que si ni que no porque no lo sé supongo que habrá casos que sí y supongo que habrá casos que no como casi siempre ocurren en estos casos ahora bien

que ningún cooperativista de ninguna de las dos cooperativas pueda aducir o alegar que se le ha engañado

estas emisiones se aprueban dentro de las asambleas de cada una de las cooperativas y por lo tanto son los propios cooperativistas los que aprueban

en este caso de los bonos o de las obligaciones o de los productos financieros que decidan aportar y en las condiciones que lo hacen desde luego los señores cooperativistas

podría alegar que las aportaciones que él compró son fraudulentas primero porque él aprobó que esas aportaciones fueran en esas condiciones

esas aportaciones y por eso nosotros

que la transacción a la que se ha llegado sorprende que en este caso aquí todo el mundo quiera pasar de rositas dando el nombre de las empresas sorprende bastante desde esa parte verdad no sé aquí la gran banca es la que tiene la culpa de todo

y el partido nacionalista vasco que nos dice que ha mejorado el acuerdo al que llegamos en madrid para las preferentes de los bancos que recuerdo y solo por recordar

para autofinanciarse ellos y evidentemente muchos de ellos engañando no a mucha gente sino a casi todo el mundo a la hora de obtener

que no es lo que ha ocurrido en este caso y yo señor

cuando se detectan fraudes usted nos dice que lo que hay que venir es al parlamento a modificar las leyes no

incluso en el juzgado porque si se detecta un fraude es porque se ha incumplido alguna normativa legal reglamentaria de todo tipo y por lo tanto para eso están los organismos que tenemos denuncias

algunos sabía hasta exactamente el número de miles de afectados yo conozco veinte casos de denuncias veinte

y otros veinte que lo han hecho en el país vasco y no conozco más vascos ninguno en el juzgado no conozco ningún otro caso

entonces es complicado que un parlamento se meta a resolver un problema que digamos los instrumentos que el estado de derecho tienen previstos no han actuado todavía porque no se han puesto en marcha

es que toda persona que se considere en este caso que evidentemente le han engañado a la hora de colocarle las aportaciones

incluido el juzgado y si el fraude es doloso incluido el juzgado de lo penal lo que nos sorprende un poco en este caso

sin que se haya intentado solucionar lo que sea solucionable en las vías normales que para eso nos las tenemos dotadas hace tiempo en este caso el instituto vasco de consumo y

si alguno de ustedes me convence de lo contrario durante el siguiente trámite pues a lo mejor modificamos nuestro voto que en este caso va a ser el de la abstención

presidenta a nosotros sí que nos parece que es un asunto que

ser traído a este parlamento sacarlo a la plaza pública darle toda la publicidad que sea posible y que tratemos entre todos de buscar

efectivamente pasaron varios meses nadie decía nada parecía que era un asunto que no interesaba a nadie y nosotros no quisimos estar junto al resto de partidos políticos o junto a algunos partidos políticos que parecían pretender que de este asunto

pedir las comparecencias escuchar a distintas entidades financieras escuchar a los afectados

al consejero correspondiente y traerlo a este parlamento me parece que es por lo tanto absolutamente fundamental e indispensable y estoy convencido que el hecho de que se debata aquí ya es un paso adelante para buscar la mejor solución posible a miles de personas engañadas el señor tellería hablaba de unas cuantas personas que quizás habrían sido engañadas nosotros pensamos que son miles de personas las que han sido engañadas

una información falseada y por lo tanto estamos seguros que el hecho de traer este asunto aquí ya es un paso para que se puedan dar y aplicar las mejores soluciones posibles

o no tan curiosa la posición de eh bildu en este asunto porque

de totalidad efectivamente proponía solicitar a las entidades financieras y empresas que hayan emitido o comercializado activos financieros de riesgo o productos financieros similares que devuelvan su inversión original a los clientes que adquirieron dichos activos cuando así lo requieran y en caso de que hayan declarado que los compraron sin conocer los riesgos que comportaban

laminada por razones que no llegamos a entender del todo pero lo cierto es que rápidamente el grupo eh bildu echó un capote al grupo nacionalistas vascos y firmaron rápidamente no sé si con nocturnidad con nocturnidad no creo pero con inusitada rapidez una transaccional que lo que pretendió fue zanjar este debate y en lugar de plantear soluciones y ambiciosas pues básicamente dar un paso atrás para que nada pueda conseguirse nosotros en todo caso este asunto vamos a llevarlo al congreso de los diputados ya hemos registrado alguna pregunta sobre la materia porque efectivamente nos parece que esta transaccional que ustedes han firmado es una transaccional

claramente insuficiente y que no aporta una solución global a los afectados creo que obvia lo que para nosotros es muy

una comercialización engañosa generalizada no vamos a señalar a ninguna entidad financiera en concreto

y han sido varias las empresas vascas por muy solventes que sean

se pueden decir y se pueden citar pero lo cierto es esto miles de personas engañadas el señor tellería hablaba de casos concretos miles de personas engañadas miles de personas que recibieron una información incorrecta una información incompleta una información parcial

y en el mejor de los casos una información poco clara y por lo tanto nosotros quisimos traer aquí este debate y presentamos esta proposición no de ley que podía haber sido mejorada si entre varios grupos de la cámara o no sé si todos hubiéramos podido

que mejorase la propuesta original cosa que a veces suele ocurrir y en ese caso yo reconozco que nuestra propuesta original era claramente mejorable

la enmienda planteada por el grupo socialista que efectivamente es más amplia es más completa y plantea distintos asuntos que para nosotros

tienen mucho de interés nosotros pensamos que estamos ante un fraude y ante un fraude masivo se requiere una solución justa y global pero lo cierto es que esta transaccional que el grupo nacionalistas vascos y eh bildu

lo iremos comprobando en el futuro esta transaccional en concreto creo que no sirve para nada y lo cierto es que a partir de hoy miles de ciudadanos se van a sentir traicionados y dejados de la mano no de dios sino de una mayoría de parlamentarios de esta cámara

escuchándoles y seguiremos poniendo encima de la mesa este asunto ya digo que vamos a plantear también este asunto vamos a llevar este asunto al congreso de los diputados creo que esta transaccional que ustedes han firmado es una oportunidad

creo que no es ni siquiera un paso excesivamente corto sino un paso claramente insuficiente que no plantea soluciones que desde luego no plantea una solución global al fraude y que además no pide el reembolso de las cantidades invertidas para aquellos ciudadanos que efectivamente fueron engañados y por lo tanto insisto la pregunta que deberían

escuchándoles es qué hay detrás de esta propuesta de transaccional firmada entre los grupos nacionalistas qué hay detrás de esta transaccional evanescente

ambiciosa qué hay detrás qué hay detrás qué es lo que le ocurre a eh bildu que suele ser tan contundente para algunos temas

de estas características y que luego sin embargo rápidamente se echa en brazos del grupo nacionalistas vascos para firmar una transaccional

sino que claramente las evita espero que la portavoz del grupo eh bildu nos explique qué hay detrás de esta firma tan sospechosa de esta transaccional

parece que algunos grupos tenían mucho interés en nuestra primera enmienda

tenemos o dejamos de tener sensibilidad hacia los afectados y afectadas sensibilidad hacia los afectados claro que la tenemos

intervención y sobre la solución que nosotros proponíamos y que en la

señor maneiro le voy a dar con toda respuesta porque sé que le preocupa mucho en las comparecencias del lunes tanto

pusieron sobre la mesa diferentes soluciones como bien he dicho anteriormente el señor prieto

por lo tanto creíamos que nosotros o nosotras como un grupo parlamentario limitarlo a una única solución no era la solución porque ellos

esa es única y exclusivamente la explicación nosotras y nosotros seguimos creyendo en la defensa de los derechos

evidentemente estaremos también atentos a cómo va este proceso sí señor maneiro

estaremos igual que usted porque es nuestra obligación es nuestra obligación

si estamos o no estamos sensibilizados estamos lo que no queremos

ponernos a decir aquí que todo el mundo es bueno o que todo el mundo es malo se trata de buscar soluciones a los afectados

que se aclare cómo ha sido la comercialización cómo se ha realizado y a partir de ahí llegar a soluciones que ellos mismos han puesto sobre la mesa ojalá

no vamos a limitarlas a una solución que nosotros creíamos que era una solución viable y que ellos no la plantearon tal cual encima de la mesa no la plantearon de esta manera por lo tanto

explicaciones por la intervención que ha tenido la primera es que

también de vez en cuando la puede expresar en una enmienda en una propuesta para que

pueda resolver y ustedes no han hecho ninguna propuesta

porque parece que son ajenos al problema y que solamente tienen la función en este parlamento de comentar las propuestas que hacemos los demás

entre todos podemos resolver algo le aclararé para su conocimiento porque lo puede mirar en las actas que el veintinueve de junio del año dos mil cuando se debatió en este parlamento la reforma de la ley de cooperativas que permite

que produce estas subordinadas el partido socialista estuvo en contra bien es cierto que lo estuvo por otras razones que se refería más a la financiación porque hombre no pensará usted que la clarividencia que solemos tener llegaba al punto de saber

unas subordinadas y que en el dos mil trece estarían

no podíamos hablar de lo que no había existido pero sí

en eso consiste también la política en anticiparse a lo que puede pasar

de lo que ya ocurre porque eso no es la política

también que entidades colocadoras de las subordinadas son el bbva el santander la caja laboral kutxabank caixa

y otros que tienen menos participaciones nosotros no vamos a significar a una entidad financiera cuando hay muchas más lo hemos dicho al principio y es más

en esta tribuna una defensa del grupo mondragón de eroski de incluso de caja laboral porque nos parece que no hay que

como únicos responsables o globalmente en este problema cuando tienen también otras actividades y por último señor damborenea decirle que fraude es un engaño y que aquí hay engaño y si hay engaño hay fraude

al señor tellería porque como el señor tellería sabe este es un producto complejo este es un producto para inversores especializados este no es un producto para pequeños ahorradores

un historial en el que nunca han entrado en productos de este tipo sin embargo

y porque alguien les ha convencido o porque en alguien han confiado para que

haciéndose cargo de este tipo de productos por lo tanto estamos ante un asunto en el que cuando decía el señor tellería qué podemos hacer nosotros en este asunto primero aceptar la realidad porque aquí hay una especie de evitar

testimonios ya muy contrastados y muy consolidados de las cosas que han pasado y que están contando pequeños ahorradores cómo puede acabar en un producto de estos

poco más allá de esas cantidades a lo largo de toda una vida

una actuación indebida y entonces qué sabemos nosotros que esto ha ocurrido qué podemos hacer nosotros posicionar a este parlamento con claridad a favor de los afectados sin prejuzgar cuál es el resultado final de ese posicionamiento a favor

algunos de ustedes lo que quieren es como ha dicho el señor tellería mejorar el acuerdo de mediación y arbitraje

en relación con las preferentes fíjese nosotros también lo queremos mejorar el partido socialista de euskadi también lo quiere mejorar se inventa una herramienta o cuando se pone en funcionamiento una herramienta también hay que hacer el seguimiento

claro ustedes que en ese sistema de mención y arbitraje

con expertos a este respecto donde quieren llevar la mediación y el arbitraje

está dando vueltas por el parlamento y está dando vueltas en la opinión pública y por la sociedad

sabe usted ya que ha estudiado tanto ya que ha hablado tanto con los bancos ya que ha hablado tanto con los afectados ya que ha hablado con todo el mundo y nos ha dado una lección aquí de hablar a través de su gobierno que para eso están en el gobierno ha preguntado si kontsumobide ha hecho alguna cosa a este respecto porque estaría muy bien saberlo señora

la réplica ha sido infinitamente más fugaz que la exposición inicial efectivamente yo no sé por qué

ustedes un marrón es un marrón que supongo que tiene solidaridad al margen

aquí que es si este parlamento hace un acto de ayuda y de apoyo a unos afectados que han sido tratados de manera

conocimientos de cuál era el producto que tenían en las manos y que sabían que mientras la economía estuviera en la especulación

pero que cuando esa economía no estuviera en esa especulación y las entidades financieras lo sabían mejor que nadie
esos productos serían prieto jauna bukatzen joan mesedez productos que les quemarían en las manos a aquellas personas

trabajar ahorrar unos pocos recursos intentar sacar un pequeño rendimiento

no tienen ni rendimientos ni el dinero invertido ni nada por qué hay que devolverles el principal y con esto termino

porque si hubiera sido un producto adecuado para esas personas esas personas podrían haber retirado en cualquier momento
ese capital y ahora no lo pueden hacer por eso hay que devolverles el principal eskerrik asko prieto jauna

legebiltzarreok bien lo que he visto en el señor maneiro y en el señor prieto es una duda

de que son miles los defraudados piensen que el fraude

y ustedes tienen la certeza no sé de dónde lo han sacado miles de fraudes y por tanto hay que actuar de una manera más contundente si son miles y tienen esa seguridad para qué va usted a madrid al parlamento qué va a hacer vaya al juzgado

nosotros no tenemos esa certeza tenemos dudas no sé si de miles de decenas o de centenares tenemos dudas y por eso pedimos un árbitro

kontsumobide lleva trabajando en este tema bastante tiempo ha emitido informes

están trabajando en el tema nosotros no le hemos dicho a kontsumobide como si pasara por la calle y se lo damos y no supiera lo que le estamos encargando

trasladando solvencia para intentar trabajar ese tema por supuesto no tenga ninguna duda en eso sí tenemos certeza en otras cosas tenemos dudas

su proposición es mucho mejor claro nosotros de su proposición de su enmienda estamos de acuerdo en términos generales en bastantes cosas hay tres cosas desde luego que no una cuando pide a españa que legisle mire españa que legisle para lo suyo

está pidiendo cambiar la ley de cooperativas la ley de cooperativas no tiene la culpa de lo que ha pasado no tiene la culpa para nada la ley de cooperativas usted mismo menos mal que ha reconocido que efectivamente ese artículo no lo aprobaron pero era por otras razones diferentes a lo que ha ocurrido otra cosa

y por otro lado fíjese si han juzgado lo que ha ocurrido que están pidiendo en su enmienda que devuelvan el cien por ciento a todos

eso es una irresponsabilidad decir que este parlamento apruebe que fagor y eroski devuelvan ochocientos cuarenta y cinco millónes de euros a los ciudadanos que compraron sus bonos eso

por tanto pensamos que habrá que trabajar e intermediar en lo que ha pasado mire

para mi en cualquier caso no voy a intentar entrar

su tratamiento es excesivamente popularizante y está trabajándolo desde una ortodoxia que con demasiada frecuencia le lleva a contradicciones

no obstante la ortodoxia incorrectamente manejada le lleva a la contradicción y de ahí a la hipocresía

muchas gracias señora presidenta señor maneiro pasaron varios meses y

emitieron estas aportaciones han pasado muchos años han pasado desde la primera once años desde la última

no había ningún problema señor prieto nos dice usted

hemos cuando nosotros el original nos parece lo suficientemente claro y nos parece bien no lo enmendamos no es necesario hacer siempre una enmienda para decir más o menos lo mismo de lo que ha hecho el proponente a nosotros del señor maneiro nos gustaba el segundo párrafo

nosotros no estamos de acuerdo en que se devuelva el cien por ciento del capital a toda la gente que suscribió las aportaciones y le voy a decir

y las condiciones de la emisión no no a mí nadie me va a convencer que un cooperativista que ha suscrito una aportación de su cooperativa que él ha aprobado con las condiciones que él ha establecido le ha engañado alguien cuando además esa ley que ahora algunos dicen que hay que modificar

dice que tiene además derecho preferente a adquirir esas aportaciones por lo tanto nosotros no estamos de acuerdo sabemos ya

que es a los que lo emitieron y lo suscribieron y por eso en ese primer punto no estamos de acuerdo estamos de acuerdo en el segundo que en fin que lo que planteaba el señor maneiro y supongo que lo seguirá planteando pediremos la votación separada para el segundo punto que el parlamento vasco insta a kontsumobide

en qué se diferencia de la enmienda transaccional del partido nacionalista vasco

vasco y de bildu hoy estamos hablando de un problema etéreo en el que fagor no existe

las aportaciones no existen de eroski o sea aquí estamos hablando de un problema etéreo que tienen determinadas empresas y determinados ciudadanos con no se sabe qué activos financieros

y resulta que estamos hablando de un tema concreto de dos empresas concretas entonces si este parlamento intenta digamos poner solución a eso qué menos que por lo menos citar cuál es el problema intenta aplicar una solución por eso nosotros he dicho desde el principio que nos íbamos a abstener a la transacción que se ha realizado y